oztopatzea nahi dela en el plan de paz y convivencia recientemente presentado por el lehendakari

ni una sola mención a la cuestión del acantonamiento o expresado en su corolario positivo el necesario repliegue de los cuerpos y fuerzas de mando instalado en madrid sí se hace una referencia al compromiso social por la convivencia y los derechos humanos quiero entender que no mencionar a las fuerzas y seguridades

quiero pensar que no es que se evite por una mera cuestión técnica por falta de competencia en la materia porque sí que hay otras menciones dentro de ese plan

recomendaciones o iniciativas que se abordan sobre las que se carece de una competencia

quiero leer entre líneas que es porque el lehendakari se hace eco de un arraigado sentimiento popular de que esos grupos policiales no están ni invitados ni se les espera en un proceso de normalización

sería su desaparición su única lógica es el repliegue más aún en un escenario en el que carecen de funciones que pretendan justificar

más aún en un momento en que solo arrojan gasolina a un fuego que ya resulta ser rémora del pasado en el plan presentado por el lehendakari se apela al principio de realidad lamentablemente esa realidad todavía viene condicionada por algunos

por quienes desde el inmovilismo dan pasos

hoy hacemos este debate con dos personas bajo detención incomunicada dos personas que fueron sacadas de sus domicilios de noche y a punta de pistola

a malos tratos y a autoincriminaciones forzosas no voy a recurrir a la retahíla de recomendaciones internacionales que han señalado el binomio

el más reciente el dictamen del comité de derechos humanos que diecinueve años más tarde reconoce las secuelas crónicas que el mal trato dejaron

estatuaren interes orokorra larriki konprometitua dagoenean en definitiva hoy traemos una reclamación

en la sociedad vasca que se vayan que se replieguen que se disuelvan

o su nuevo destino lo que no podemos asumir es que permanezcan que se queden en los términos actuales este país no lo merece

señor barrio porque además de ser continuo límite para el ejercicio de derechos fundamentales son ariete principal para dificultar

y la convivencia en este país por eso precisamente traemos hoy a este debate una proposición no de ley que recogía en sus dos primeros puntos palabras textuales de la consejera beltrán de heredia

los verbalizó de esa manera reclamando el repliegue y si bien lo hubiesemos redactado de otra manera considerábamos que su posición era correcta

vemos que la idea está recogida también en la posición del pnv y es por eso que en cualquier caso además de la nuestra apoyaremos también la enmienda

muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos obviamente

de la iniciativa planteada por quienes a día de hoy siguen justificando y defendiendo los intereses de eta y votaremos a favor de nuestra enmienda de totalidad nosotros en esta enmienda de totalidad lo que proponemos es que este parlamento celebre anualmente un homenaje a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que a lo largo de todos estos años han sido escudos para los ciudadanos vascos y españoles

la extorsión y la persecución implacable de todos los ciudadanos que no quisieron someterse a los dictados de eta y sus servicios auxiliares aquí presentes el parlamento vasco proponemos que agradezca públicamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado su dedicación extraordinaria para mantener los derechos y la libertad de los ciudadanos y recuerde su inmenso precio pagado

proponemos que este parlamento rechace la propuesta de repliegue de la guardia civil y la policía nacional planteada en su momento incluso también por la actual consejera de seguridad

sigue siendo necesaria y porque aunque los amigos de eta no les guste euskadi

eta que no ha desaparecido y sus representantes políticos aquí presentes han intentado históricamente que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado

de su actividad terrorista y sus servicios auxiliares aquí presentes a través de la presión social acompañando y justificando los asesinatos de la banda denigrando y señalando previamente a sus víctimas e insultándolas después

eta tal y como recoge nuestra enmienda de totalidad ha asesinado a doscientos treinta miembros de la guardia civil y a ciento ochenta y tres miembros de la policía nacional a ciento tres militares a quince ertzainas

municipales a cincuenta y ocho empresarios a sesenta y ocho representantes políticos

además de profesores universitarios y otros muchos ciudadanos anónimos eta ha asesinado

a parados a amas de casa a taxistas y a todo aquel que se le interpuso entre sus disparos y su proyecto político totalitario que a día de hoy sigue siendo defendido por los representantes políticos de esa banda terrorista aquí presentes estos asesinatos

sin el apoyo político y social que la izquierda abertzale ha prestado a eta

estos asesinatos no se habrían podido cometer sin el apoyo político y social que el conjunto de la izquierda ha prestado durante décadas a eta hoy esa

aquí presentes con sus veintiuno escaños siguen defendiendo ese proyecto político que siempre ha defendido

obviamente de la ausencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado por eso proponen que se vayan eta lo hizo para imponer su proyecto totalitario y para poder campar a sus anchas

para imponer su proyecto totalitario eta que no ha desaparecido y continúa amenazante pretendió echar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado

pretende continuar ese trabajo de eta a través de las instituciones a pesar de que sigue sin condenar a eta y por lo tanto es una obviedad que no deberían estar aquí presentes

de plantear hoy aquí esta propuesta vestida de ahorro económico reducción de duplicidades y respeto al estatuto ustedes no tienen vergüenza al plantear esta iniciativa y vestirla de ese modo obviamente nosotros les décimos

que euskadi forma parte de españa y que por lo tanto los miembros de la guardia civil y de la policía nacional deben seguir estando presentes y porque además

no ha desaparecido y continúa amenazante ayer mismo se produjeron

el último servicio de la guardia civil al conjunto de los ciudadanos vascos detener a delincuentes detener a miembros de la banda terrorista por eso se lo agradecemos y por eso queremos que sigan aquí porque esta es su casa detenciones indispensables para hacer justicia

por lo tanto y en conclusión nosotros les décimos a eh bildu que no

a su propuesta y a los miembros y cuerpos de seguridad del estado que esta es su casa y que los necesitamos y que deben seguir estando presentes

y entonan el que se vaya nosotros entonamos el que se queden que se queden porque son indispensables porque son necesarios y porque

y que se vayan de este parlamento quienes siguen estando al servicio de eta es decir los veintiuno diputados de eh bildu

los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y que se vaya eta y que se vayan los testaferros de eta gracias eskerrik asko

presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi lo primero que voy a hacer en esta intervención al igual que lo hace el punto primero de nuestra enmienda de totalidad es agradecer tanto a la ertzaintza como a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado el trabajo que han realizado en las últimas décadas

porque a los socialistas vascos en democracia no nos ha sobrado la labor de ninguna de esas policías porque entre todas ellas con la ayuda internacional y con la colaboración de la mayor parte de la sociedad vasca hemos logrado por fin que en este país la violencia propia la autóctona la de sello inconfundible haya tenido que cesar en su actividad terrorista

desde que se instauró la democracia tanto la guardia civil como la policía nacional han sido cuerpos que se han jugado la vida por defender un estado democrático

en una dictadura totalitaria hoy eh bildu

que es una iniciativa racional casi técnica con alusiones al marco estatutario quién lo diría pero no nos vamos a dejar engañar porque lo que pretenden

de las que actúan en todo el estado y de la que tiene ámbito autonómico es cierto que en la justificación de la proposición no de ley que debatimos pasaron del que se vayan

las competencia que el mismo adjudica a los cuerpos de seguridad del estado pero hoy

lo ha dejado claro el portavoz de eh bildu de cuáles son las verdaderas intenciones ha vuelto a repetir el que se vayan y tiene y pretende la misma justificación

que siempre han mantenido para tratar de menospreciar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que actúan en este estado de derecho

para los socialistas vascos el repliegue de las fuerzas de seguridad del estado no es una prioridad máxime cuando como hemos podido comprobar hace pocos días en nuestros pueblos

que pertenece a eta lo dijimos cuando la consejera de seguridad planteó de manera propagandística el repliegue criticamos en ese momento a la consejera porque no hizo lo que tenía que hacer

su opinión sobre la presencia de las fuerzas de seguridad del estado en euskadi insisto hay cosas más importantes que decidir en este país más allí del repliegue de las fuerzas de seguridad del estado que por otra parte no cuestan un solo euro a las arcas vascas lo urgente es como acordamos las medidas necesarias para superar la crisis qué medidas hay que tomar para la reactivación económica y la creación de empleo cómo vamos a defendernos

esto es lo que los ciudadanos y ciudadanas vascas esperan de nosotros en cualquier caso

de que los socialistas respetaremos y aplaudiremos los acuerdos a los que se puedan llegar en el seno de la junta de seguridad pensamos que ese es el lugar donde se debe plantear la cuestión sin efectos propagandísticos sin retos innecesarios con respeto y con argumentos

es la referencia en esa negociación conclusión

lo que les pedimos es que cooperen y se coordinen para garantizar la seguridad de los ciudadanos

gustado llegar a un acuerdo de transacción con el grupo que apoya al gobierno ya que su enmienda

fundamentalmente en aplicar el estatuto de autonomía y el ordenamiento jurídico vigente no ha sido posible porque se negaba el grupo nacionalistas vascos

para acabar con la violencia el pnv en esta ocasión ha preferido contar con el voto de eh bildu a negociar con nosotros una transacción

pretendía mantener las dos cuestiones el reconocimiento a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y la negociación en la junta de seguridad

mediante el proceso de actualización del régimen foral previsto en la disposición adicional primera de la constitución corresponderá a las instituciones del país vasco

el régimen de la policía autónoma para la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público dentro del territorio autónomo

los servicios policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario como la vigilancia de puertos aeropuertos costas y fronteras aduanas control de entrada y salida en territorio nacional de españoles y extranjeros régimen general de extranjería extradición y expulsión emigración e inmigración pasaportes y

armas y explosivos resguardo fiscal del estado contrabando

erabaki honen ondorioz guardia zibilaren eta polizia nazionalaren atzera egitea gauzatu beharra zegoen el estado español señorías tiene la ratio policial más alta de europa según los datos últimos datos del sindicato unificado de policía

un ratio superior todavía seis coma nueve agentes por mil habitantes se trata de la proporción más alta de la unión europea y salvo excepciones de difícil comparación de todo el mundo de hecho dobla la media de la mayoría de los estados miembro por ejemplo en alemania la ratio sería de dos coma nueve policías por cada mil habitantes en francia el tres coma cinco en irlanda el dos coma seis en bélgica el tres coma siete y en finlandia

egindako segurtasun batzordean bertan estatuaren ordezkaritzak definitzen zuen modu horretan la sustitución progresiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado por la policía autónoma del país vasco para el ejercicio de los cometido que ha esta corresponden lo que hace preciso abordar la acomodación del contingente policial humano y material

sin embargo señorías la continua presencia de la actividad terrorista de eta hasta hace unos meses y por qué no decirlo algunas resistencias políticas aceptar las consecuencias que suponen la misma existencia de la ertzaintza como policía integral han convertido el repliegue o la adecuación en un tema tabú como hoy mismo estamos pudiendo comprobar

cuestión sin que sin solución de continuidad alguien ponga sobre la mesa las víctimas asesinadas por eta

o las presuntas obsesiones nacionalistas claro está siempre por parte de los mismos pretendiendo en realidad a través de la confusión de debates y el enredo no entrar al meollo de la cuestión que no es el de otro que el del respeto a la legalidad

y la defensa del marco propio de autogobierno aprovechando el viaje además en este caso para sacudir a la consejera en definitiva para algunos se trata una vez más

porque es de eso de lo que el pnv pretende hablar hoy y esa es la razón y el contenido de nuestra enmienda de totalidad

y muchísimo menos a dar ninguna cobertura ni explicación a los asesinatos de los doscientos treinta miembros de la guardia civil y los ciento ochenta y tres policías nacionales cometidos por eta

en numerosas ocasiones basta ya por tanto señorías de usar este tema como el baldosinin que sirve para blanquearlo todo también las posiciones políticas de falta de compromiso

es cierto eta ha condicionado mucho negativamente aspectos importantes de la operatividad cotidiana de la ertzaintza pero a pesar de ello

palpable en términos de despliegue operatividad y servicio

el despliegue geográfico y el desarrollo profesional de los recursos humanos y técnicos de una policía cercana profesional e integral

a pesar de las dificultades añadidas que ha tenido que superar y esa realidad se ve se siente y se usa una red de veinticinco comisarías estratégicamente expandidas en la geografía vasca

en todos los ámbitos operativos que abarca el concepto de policía integral formación de nuevos agentes configuración de unidades de elite

investigación policía científica inteligencia son conceptos que sostienen y dan solidez a la estructura operativa de un servicio policía integral y todo ello se ha logrado a pesar

el despliegue policial en el país vasco está condicionado a la desaparición de eta eta atzera egiteari buruz

reajuste continuo de las plantillas en el que entre otros factores se tiene en cuenta la conflictividad social y determinadas formas graves de delincuencia entre ellas el terrorismo una vez que este desaparezca decía el señor mayor oreja se tendrá en consideración en este reajuste

no hay institución pública que no se cuestione su eficiencia con una formula tan sencilla como la de recursos económicos utilizados necesarios para el servicio que ofrece a una población determinada y de esto es también de lo que toca hablar en términos de seguridad la seguridad percibida y real

es en este ámbito en el que hay que empezar a platear la adecuación y el repliegue de las fuerzas de seguridad del estado la excusa de una determinada actividad terrorista

las necesidades de seguridad que percibe y demanda la sociedad actual se mueven ya en otros parámetros y ámbitos de actuación hace casi dieciocho años que concluyó el despliegue territorial de la ertzaintza el desarrollo de su proceso de despliegue funcional

presentes en el territorio de la comunidad autónoma mediante la identificación de una serie de criterios técnicos reales y compartidos que sirvieran de base a un documento de cierre dinámico del proceso una situación que acabe con la inflación de policías las duplicidades y como gusta decir al señor maneiro los despilfarros ekintza terroristen behin betiko amaieratik

gracias señora presidenta bien volvemos a repetir que no a reproducir un debate que ya tuvimos el año pasado en esta cámara

nuestros argumentos van a ser parecidos desde luego los de los proponentes no

por lo menos ha sido sincero en su intervención vergonzante vergonzoso pero sincero porque usted en la proposición intentaba plantearla en dos vertientes

y luego una segunda en un plano estrictamente político y hoy aquí con expresiones absolutamente vergonzosas

exclusivamente en ese punto que a usted le interesa que es el punto político

por parte del partido nacionalista vasco se han intentado dar esas razones económicas pero que ya se ha visto que no son más que una cortina de humo que lo que pretende es esconder y camuflar los verdaderos anhelos para disipar cualquier tipo de duda sobre la legalidad y la procedencia

la constitución en el artículo ciento cuatro la ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en su artículo uno y tres el estatuto de gernika en su artículo

ofrecen el paraguas legal necesario para la presencia de las fuerzas

a la señora consejera en la primera comparecencia cuyo interés en aquel momento parecía estar más que en explicar las líneas generales de la política a llevar por su departamento

reivindicación nacionalista de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado abandonen euskadi

falsas una que eta ha desaparecido cuando no ha sido así y otra que parece que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado solamente están fundamentadas por la existencia de eta

eta no ha desaparecido y la guardia civil y la policía nacional tienen competencias en todo el territorio nacional lo que exige su presencia en todo él y euskadi aunque algunos no les guste forma parte de ese territorio nacional y por tanto su presencia aquí está absolutamente justificada no hace falta que nadie les invite a estar

en cualquier caso y volviendo a la iniciativa propuesta por bildu desde su perspectiva se puede entender que ustedes quieren que abandonen las fuerzas de seguridad del estado euskadi

no nos engañemos es la presencia de cualquier cuerpo policial les sobran todos incluida porque lo que ustedes es pretenden implantar un modelo de policía a modo de cuerpo de alguaciles

ustedes consideran que cualquiera la policía nacional la guardia civil

lo que hace no es garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos lo que hace es

se lo hemos oído en muchas ocasiones ustedes apuestan por un modelo de policía que practique la impunidad ante el enaltecimiento del terrorismo que mire hacia otro lado

que no persiga a quienes amenazan extorsionan o matan y en definitiva que sea absolutamente tolerante y permisivo

que tratar de vulnerar los derechos y libertades del conjunto de los demócratas y todo todo lo que no se encuadre dentro de esa filosofía policial que ustedes tienen

provocación bildu no quiere una policía que persiga el delito sino que proteja al delincuente lo que ha hecho en muchísimas ocasiones es referirse a la policía con términos absolutamente peyorativos y seguro que más de uno de ustedes habrá coreado aquello de presoak kalera

apuestan por un modelo policial que sea permisivo no solo con los vítores sino también con la plasmación concreta de ese otro lema tantas veces entonado de jotake irabazi arte pero es evidente como decía con anterioridad

histórico es compartido por el conjunto del nacionalismo planteamiento que no nos engañemos señor iturrate no nos engañemos cabe absolutamente en ese otro lema que se coreaba en todas las verbenas del que se vayan se vayan y no voy a continuar y frente a este planteamiento desde el grupo popular queremos realizar no solo

sino también un reconocimiento al conjunto de las fuerzas policiales que han luchado en primera persona contra el terrorismo de eta y lo hacemos porque nos parece un ejercicio de justicia de decencia ética y de democracia aunque algunos esa palabra no la conozcan nuestro agradecimiento y reconocimiento lo es a la totalidad de los cuerpos policiales pero aquí nos vamos a referir a los que son objeto de la iniciativa a la guardia civil

como se ha dicho aquí doscientos treinta agentes de la guardia civil y ciento ochenta y tres de la policía nacional han muerto a manos de eta muchos de ellos es verdad provenientes de otras partes de españa que fueron asesinados recién cumplida su mayoría de edad que venían aquí

en ataúdes sacados por la puerta de atrás lamentablemente

el desamparo institucional y el desarraigo social manifestado durante décadas hacia los policías nacionales y las guardias civiles cuando eran víctimas del terrorismo

con el que eran despedidos esas personas representa uno de los capítulos que acumula una mayor carga de insensibilidad en la historia de este país y no se puede hablar

creo que esa expresión señor iturrate no le honra en absoluto es

para preparar esta intervención he rememorado los atentados de eta y es que hay que rememorarlos hay que rememorarlos es duro y cuesta pero hay que rememorarlos porque son imágenes expresión del terror en estado

del terrorismo y desde luego que a fecha de hoy

no solamente de no condenar sino que

eso sí que algunos desde luego traten como han tratado ustedes de contraponer en su proposición la actividad armada de eta y luego diré

en defensa de los derechos y libertades de todos los vascos es indignante

sin condenar estos atentados y como decía ustedes

porque ustedes son maestros en la manipulación del lenguaje

con ello no solamente no condenar las acciones de eta sino parece que rebajar la gravedad de las mismas y queremos decirle que no vamos a tolerar manipulaciones lingüísticas

eran terrorismo terrorismo en estado puro en el sentido más literal del término porque

yo comprendo que ustedes ahora que se están intentando poner la careta aunque cada vez se les vaya cayendo más la careta de demócratas les cueste llamar terrorismo a lo que durante tantos años han estado jaleando pero era terrorismo y lamentablemente como les decía la amenaza de eta sigue latente porque en el último comunicado no podemos esbozar ni el más mínimo atisbo

a tenor del tono amenazante utilizado advirtiendo de las consecuencias negativas que podría acarrear la firmeza del gobierno de no ceder a su chantaje noesbozamos ni el más mínimo intento de realizar enmienda a la totalidad

de mostrar un sentimiento de culpa ni la más remota posibilidad de mostrar un sentimiento tan humano como es al arrepentimiento no lo vemos ni en eta

se lo he dicho en muchas ocasiones es mucho más que ponerlo encima de un papel desde luego sin ánimo de que usted lo considere un baldosinín señor iturrate creo que el terrorismo ha creado

ha producido grandes heridas que algunos intentan suturar con falsas punzadas

persiguen poner el contador a cero instalar esa paz

basada en el olvido y en la amnesia colectiva una paz desmemoriada una paz abrazada a la indignidad a la degradación

basada en no reconocer a las víctimas del terrorismo pretenden una paz en la que se olviden las acciones de eta lo que pretenden es que los demócratas

pero no cuenten con el grupo popular para ello porque nosotros

en la memoria en la dignidad y en la justicia sin equidistancias creemos en un final del terrorismo sustentado en un relato fiel

que lejos de conllevar el que se vayan a la guardia civil y a la policía nacional lo que conlleva es un reconocimiento a la labor realizada
y un reconocimiento y un agradecimiento por su defensa de los derechos y libertades de los vascos nada más muchas gracias eskerrik asko

bien ustedes han entrado en la vertiente más épica más rancia apelando además a esos valores de

más fuera de tiempo y de lugar podíamos haber hecho algo parecido recordando las ejecuciones extrajudiciales las torturas las tramas verdes y azules de los gal

a través de estos cuerpos están ahí y tendremos la oportunidad de hablar de ello largo y tendido señor unzalu ayer su compañero de bancada el señor ares me decía conozco su pasado no sé qué quería decir con ello si suponía que así

de mi pasado quién le diría a usted que pasaba de combatir estos cuerpos

a darlos absoluto cobijo en un momento además cuando se vislumbra que son instituciones depuración sin moverse ni un milímetro de donde siempre estuvieron cierto que invoco el artículo diecisiete del estatuto porque conozco la legislación y porque conozco el marco no porque lo comparta sin moverme de donde estaba ni de donde estoy sí quería abrir

que intentaré resituar entendemos que el objetivo no es el mero hecho de que se vayan unas fuerzas de policías sino que el debate real es el que esta sociedad demanda implementar un nuevo modelo de policía que debe estar al servicio de este país a la medida de lo que hoy necesita

sino porque representan precisamente lo contrario del modelo policial que la sociedad demanda porque reproducen y reflejan todos esos valores

de control social de actuación represiva y reactiva de distancia de acantonamiento de opacidad de superioridad y de soberbia que el ciudadano

características que ustedes hoy dan bien han glosado si bien involuntariamente

que el desapego hacia esa policía de la ciudadanía fuera absolutamente el mismo no habríamos conseguido absolutamente nada cierto que encuentra el rechazo de la mayoría de la ciudadanía y precisamente porque ha operado en contra de la absoluta mayoría de la ciudadanía

eragin déjenme que les lea un párrafo

en los últimos años se han producido millónes de identificaciones por todos los cuerpos de seguridad sin razón alguna originando molestias a los ciudadanos y con posible vulneración

de los mismos no se puede actuar identificar o registrar a ningún ciudadano sin una sospecha fundada de que ha cometido un delito o pueda cometerlo

y por lo tanto deben prohibirse me podrían

pero es un informe un modelo de seguridad para el siglo veintiuno asociación unificada de guardias civiles sindicato unificado de policía

y policías nacionales pueden tener posiciones más sensatas más racionales que algunas de las que ustedes defienden apelan nuevamente al pasado

retrovisor llegará un día próximo cercano en que

vía libre tras haber sido detenidos en un control de carretera

más lejanos cada vez más pequeños besterik ez eskerrik asko

gracias presidenta me reitero en que tanto la iniciativa como el discurso de eh bildu es rancio y es absolutamente vergonzoso

inaceptable e intolerable que las cosas que ustedes dicen habitualmente en esta cámara puedan decirse

sabemos lo que ha ocurrido y hemos tenido que escuchar todo tipo de barbaridades ustedes siguen planteando y siguen defendiendo esas barbaridades a nosotros nos sigue pareciendo

que ustedes sigan sin condenar a eta que es una realidad de hoy porque no ha desaparecido nos parece absolutamente vergonzoso que ustedes sigan sin exigir a eta que desaparezca nos parece absolutamente vergonzoso que ustedes que no son demócratas ni respetan el estado de derecho aquí de darnos lecciones al resto de parlamentarios que sí somos demócratas nos parece absolutamente vergonzoso la utilización del lenguaje

a una banda terrorista o llamar acciones armadas a lo que es terrorismo a lo que es asesinato

todo esto es absolutamente vergonzoso inaceptable e intolerable en un parlamento es absolutamente vergonzoso que ustedes sigan justificando las acciones

es absolutamente vergonzoso inaceptable e intolerable que ustedes sigan criticando detenciones de delincuente como han hecho hoy aquí otra vez lo hicieron ayer mañana y pasado mañana es absolutamente inaceptable y antidemocrático que haya un partido político que cuestione y critique la detención de delincuentes y es absolutamente inaceptable y vergonzoso no solamente que lo digan y que lo hagan sino que monten circos mediáticos para intentar que colaboradores

sean detenidos todo esto es lo que es absolutamente inaceptable vergonzoso en una sociedad democrática esto es lo que es absolutamente inaceptable

nos da absolutamente igual los votos que ustedes reciban porque ustedes no tienen calidad democrática mientras sigan manteniendo ese discurso y mientras sigan defendiendo las acciones criminales

no nos den lecciones al resto y es absolutamente vergonzoso que ustedes sigan sin condenar las torturas cometidas por eta durante toda

inaceptable y antidemocrático que ustedes sigan sin condenar las ejecuciones cometidas por eta ejecuciones

mujeres y niños que ustedes absolutamente

en fin de ahí nuestra enmienda homenaje

del estado por su gran trabajo realizado durante largas décadas agradecimiento público a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado desde luego incluyendo a la ertzaintza agradecimiento público

a euskadi por los servicios prestados a los ciudadanos vascos y desde luego rechazo absoluto del que se vayan tienen que seguir estando aquí porque euskadi es españa

eta no ha desaparecido por ambas cosas pero porque euskadi forma parte de españa y por lo tanto esta es también su casa esta es también la casa de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado por eso obviamente nosotros votaríamos a favor de nuestra enmienda de totalidad nada más y muchas gracias

de las garantías democráticas a la aceptación del estado de derecho en su plenitud

un tránsito de democratización un tránsito que yo les invito a que ustedes lo hagan y esto en democracia como he dicho antes tiene que ver con la defensa de las leyes y tiene que ver con la defensa de las personas que garantizan ese cumplimiento de las leyes esto es y nada más en democracia es así la aceptación de las leyes y sobre todo en democracia

es la vida de las personas también también la de los policías bien volviendo al debate que nos traía sobre repliegue retirada yo creo que si invocamos el artículo diecisiete del estatuto de autonomía

porque ahí quizás nos podríamos poner de acuerdo aquí hablar de repliegue desde mi punto de vista es una contradicción con leer el artículo

leer el artículo diecisiete como venía la justificación

quiere decir que no se puede hablar de repliegue no se puede hablar de retirada sino de lo que hablaremos es de adecuación bien

los socialistas vascos hemos defendido siempre defendemos y seguiremos defendiendo el carácter integral

he dicho en mi primera intervención y lo reitero que nosotros aplaudiremos cualquier acuerdo que se llegue en el seno de la junta de seguridad

antes ese es el ámbito en el que se tiene que decidir la adecuación en función del artículo diecisiete y de las circunstancias generales

la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en nuestra comunidad autónoma pero como he dicho en mi primera intervención en estos momentos hablar exclusivamente de adecuación hablar de que trasladar hablar de trasladar este

o este asunto de la adecuación a la junta de seguridad desde nuestro punto de vista no es justo

con los policías que durante tantos años han tenido que sufrir la violencia en este país

han dado su vida por defender las libertades de todos nosotros las libertades de todos los demócratas por eso insisto en lo que decía al principio para nosotros

a un acuerdo con el partido nacionalista en el sentido de reflejar las dos cuestiones básicas para nosotros como es el reconocimiento a quienes han durante tantos años defendiendo las libertades en este país y posteriormente que en función o en referencia al artículo diecisiete del estatuto se adecue en el seno de la junta de seguridad la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado nosotros no vamos a votar a favor de la enmienda del partido nacionalista porque no recoge comohe dicho esto que nosotros consideramos que es importante que es fundamental que se haga que es

nos abstendremos en la enmienda de upyd y votaremos lógicamente a favor exclusivamente de la nuestra muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna

presidente andrea ya sabía yo que íbamos no a terminar sino que para algunos íbamos a comenzar hablando de lo de siempre porque

o como quiera señora llanos se trata de utilizar lo que ha sido sí es verdad la gran razón

pero también la gran coartada y está siéndolo hoy y la están utilizando como la gran coartada para impedir hablar de lo que realmente estamos hablando hoy por mucho que levante la voz señora llanos por mucho que sobreactúe que actúe con impostura no van a conseguir que digamos lo que ustedes quieren que digamos pero tampoco lo que ustedes dicen que décimos

hemos venido a decir aquí que cada uno a lo suyo que se respete la legalidad y si no les hiciese sarpullido la palabra zapatero pues diría que zapatero a tus zapatos

que usted prefiera que hablemos de lo otro porque así no le obliga usted a retratarse porque a usted no le obliga así a

pues muy bien ya sabemos que es su estrategia pero no nos mezcle y sobre todo no lo haga

con la que usted lo ha hecho confundiendo la estrategia del partido nacionalista vasco en relación con eta y con la paz en este país con la que pueden tener

ha hablado refiriéndose a nosotros o incluyéndonos a nosotros que la paz abertzale porque el partido nacionalista vasco es un partido abertzale

basada en la indignidad en el cierre de filas mire usted sabe que eso es mentira sabe usted perfectamente que eso es mentira es consciente de ello

multitud de declaraciones en este parlamento y en la calle hemos compartido en el parlamento reflexiones conclusiones y la más reciente las conclusiones de la ponencia paz y convivencia de la legislatura pasada ratificada

yo no sé para usted para ustedes qué es el compromiso con la palabra dada y el compromiso con los textos firmados pero sí sé lo que supone para el partido nacionalista vasco

y los documentos firmados son ley por lo tanto señora llanos por mucho que sobreactúe no y no le admito y por supuesto dialécticamente hablando que usted pretenda dudar de lo que nosotros décimos cuando hablamos

decía hemos compartido con ustedes muchas pancartas y muchas declaraciones y muchos acuerdos parlamentarios en contra del terrorismo incluso este partido antes que ustedes antes que existiese la constitución española y el propio estatuto de autonomía y su artículo diecisiete que es de lo que estamos hablando hoy

este partido el partido nacionalista vasco llamó a la ciudadanía vasca a las calles

señora llanos antes incluso de que su partido el partido originario que dio origen al actual partido popular

por lo tanto señora llanos yo entiendo que usted haga ese discurso pero no se pase en su sobreactuación

económicas son escasas yo estoy convencido de que son reales yo admito que nos haga un juego de intentar despistarnos con la cobertura jurídica

por lo tanto le repito no vamos a decir lo que usted dice que décimos yo he dicho

se lo pasaré luego para que puedo comprobarlo en mi primera intervención

hablar de repliegue de adecuación o como decía el gobierno español en la junta de seguridad del año mil novecientos noventa sustitución progresiva o acomodación me da igual

y que no utilicen el tema para no comprometerse con lo que hay que comprometerse con el cumplimiento íntegro del estatuto de autonomía efectivamente

unas competencias listadas tasadas estrictamente en el artículo diecisiete del estatuto de autonomía de gernika que es una ley orgánica si yo no he dicho que se tengan que marchar

y calles de euskadi eso y otras muchas cosas que usted y yo hemos comentado de sus votantes han cantado también eso y el voló voló y tantas otras cosas pero en este parlamento no estamos en una verbena señora llanos por mucho que usted pretenda

voy a empezar gracias de nuevo señora presidenta diciendo el sentido de nuestro voto vamos a votar afirmativamente a la enmienda

vamos a votar a favor de la del partido socialista porque evidentemente compartimos el primer punto y el segundo punto que habla de las actuales circunstancias que ya he dicho que son

afirmativamente y voy a empezar luego me referiré

con el partido nacionalista vasco señor iturrate de verdad que me ha sorprendido y he de decirle que no gratamente

es que usted habla claro que sí ha hablado de razones económicas ha hablado de normalización ha hablado de competencias que son cortinas de humo usted al menos no ha dicho lo que el señor martínez dijo aquí la otra vez se van a ir sí o sí

se van a ir sí o sí usted eso hoy se lo ha evitado y créame

usted usted se ha incluido usted ha incluido al partido nacionalista vasco yo cuando hablaba de paz abertzale y además estaba mirando a estos señores a esa paz desmemoriada usted se ha incluido usted sabrá porqué yo no te

usted me conoce desde hace mucho tiempo y sabe que siempre en estos temas intervengo así y con la misma contundencia siempre y desde luego yo tampoco le voy a admitir a usted no le voy a admitir a usted referirse al pasado terrorista de eta y a las víctimas de eta como una excusa como un baldosinin o como la tinta del calamar no

porque lo que no se puede hacer no se puede hacer es obviar el pasado que es lo que algunos quieren y desde luego ustedes durante mucho tiempo

como la despedían y tuvieron un olvido absolutamente institucional en aquellas instituciones gobernadas por usted

sí pero lo que me preocupa lo que me preocupa y créame mucho es esa involución que estamos viendo en sus discursos y en sus posturas es una muestra de ello porque que usted se refiera a las víctimas del terrorismo como

utilizándolos como coartadas de verdad es preocupante no le voy a hablar yo no me voy a referir en términos como usted ha hecho de mí de mezquindad pero es créame

lo de los términos lingüísticos de verdad que mírenlo mírenlo

debate pausado a decir que la guardia civil y la policía nacional arrojan gasolina al fuego que se está apagando en el país vasco que son enemigos de la paz que se llevan a la gente de noche y a punta de pistola

ustedes a eso le consideran un debate pausado

háganselo mirar y ustedes como siempre cuando hablan de sociedad vasca

es la que vota a su coalición la única

los votantes del partido popular no quieren que la guardia civil y la policía nacional esos no son sociedad vasca para usted esos no son sociedad vasca eso es su flexibilidad es su admisión de todas las opciones eso es su pluralidad política de verdad

sino mírese también los conceptos y se lo he dicho modelo policial pero es que ustedes no quieren la policía nacional y la guardia civil y la ertzaintza que ustedes quieren

pues no lo sé de qué pasado del pasado de los que algunos que están ahí sentados que jaleaban a eta de ese pasado está usted orgulloso yo no lo estaría no lo estaría y desde luego yo de verdad ustedes se lo he dicho en mi primera intervención claro que no están orgullosos de su pasado porque no pueden estarlo y lo que quieren es taparlo que se nos olvide

quieren ustedes hacer contar una cosa que no sucedió porque aquí lo que ha habido es terroristas que ponían bombas y mataban gente y policías nacionales y guardias civiles que morían

o con esas bombas ese ha sido el pasado y no es para estar orgulloso y mire no crea que me quiero escapar

desde el grupo popular condenamos las torturas y desde luego ponemos y décimos

no las de ese manual del buen terrorista las de verdad que las denuncie y que a los que las hayan cometido les condenen porque nosotros condenamos las torturas

que condena todas las acciones terroristas de eta cuando lo haga podrá
empezar a plantearse darnos lecciones de democracia mientras tanto ni una nada más muchas gracias eskerrik asko

egun on guztioi hace quince días interpelaba a la consejera de desarrollo económico y competitividad sobre sus planes

que los socialistas estamos verdaderamente preocupados por el desempleo por la situación económica

la consejera me respondió y por eso estamos aquí de nuevo a ver si entre todos los grupos políticos de esta cámara logramos proponer algo que continúe impulsando suficientemente

señora consejera se deduce claramente que este año habrá un parón en ese impulso

porque es imprescindible ser competitivos para poder mantener el empleo y la actividad de las empresas y para ello es imprescindible impulsar

para conseguir una industria competitiva con productos de alto

para enmarcar dónde estamos voy a recordar algunos datos de la pasada legislatura que también cité el otro día el gobierno socialista puso en marcha programas y reforzó otros

y el plan de ciencia tecnología e innovación dos mil quince que incluye el objetivo de alcanzar una inversión total pública y privada del tres por ciento del pib en dos mil quince los avances son conocidos

que engloba investigación innovación desarrollo internacionalización destinándose seis de cada diez euros del departamento

que supusieron el dieciséis coma dieciséis por ciento de los fondos recibidos de toda españa aunque nuestro pib es solo el seis por ciento del español etorgai

y dos mil catorce hay que tener en cuenta que cada euro público en este programa moviliza dos coma cinco euros privados lo que suponen ciento cinco millónes de euros ahora nosotros esperamos que ustedes continúen esta senda porque hace falta

y la internacionalización de nuestras empresas para tener futuro y la verdad es que las declaraciones del gobierno van en este sentido pero las actuaciones lo contradicen porque reducen la financiación para esas políticas fíjense en el proyecto de presupuestos para dos mil trece que el gobierno retiró los fondos para el departamento para el área de la industria disminuyen un veinticinco coma nueve por ciento noventa y nueve millónes de euros

y de otro en ese presupuesto para dos mil trece se reducía de manera muy importante el apoyo a los agentes de la red vasca de ciencia tecnología e innovación y se eliminaban programas que daban cobertura a

tanto el lehendakari como la consejera anuncian el apoyo a la política industrial y de competitividad el impulso a la innovación también

que el gobierno había previsto para dos mil trece hacen lo contrario vamos a ver algún caso significativo

disminuyen ochenta y ocho millónes respecto a dos mil doce

y de los centros tecnológicos todo englobado en tres grandes apartados el pesi desarrollo e innovación a las tic que baja un sesenta coma tres por ciento

un veintiocho coma cuatro por ciento y el de innovación y estrategia de competitividad que disminuye un sesenta y dos coma sesenta y ocho por ciento solo en tecnología ya se quitan cuarenta y cuatro millónes así que todo el dinero destinado a lo que es importante disminuye de forma drástica y yo le preguntaba a la consejera que cómo lo va hacer entonces el gobierno en su respuesta no hubo compromiso de mantener al menos la financiación completa del dos mil doce

asuntos otro caso fundamental es el fondo de innovación que se reduce a la mitad perdiendo treinta y uno millónes precisamente el fondo donde está la investigación básica

tic y parte de la investigación estratégica etortek y etorgai o la reducción del cuarenta y tres por ciento en el programa gaitek

de nuevos productos también por ver la magnitud del desastre en su conjunto me refería que conviene fijarse en que la memoria del presupuesto fallido incluyen como objetivo la ejecución del plan de ciencia tecnología e innovación dos mil quince se trata de llegar

pero cómo lo va a lograr si el fondo estratégico de innovación que debería tener este año setenta millónes

le ha asignado treinta y cinco es una contradicción enorme dice que mantiene el objetivo y reduce prácticamente a la mitad la dotación de un fondo muy importante para ese fin porque promueve la inversión privada en la proporción uno a tres además no solo que haya recortes también se eliminan programas por ejemplo un programa que apoya la investigación estratégica para mejorar la competitividad de las empresas destinado directamente a los agentes de la red de ciencia tecnología e innovación y lo quitan lo quitan sí la consejera aseguró que lo mantenía pero lo único que mantiene

pero no ha presupuestado nada para el año que viene quiero pensar que es un despiste en cualquier caso

para este recorte o eliminación o saiotek

y a las actividades de la universidad con criterio empresarial con este panorama otro problema importante es que parece que el departamento no sabe o no dice completamente lo que está haciendo cuáles son sus intenciones hace quince días la consejera me respondía

se entendía que se refería a mis argumentos respecto a que la prórroga presupuestaria

no es más consejera que una decisión política es priorizar pero la consejera añadía

no es el presupuesto de dos mil doce el que se prorroga es el presupuesto ejecutado decía

pues no señora consejera léase la ley

se prorroga el presupuesto actualizado se haya ejecutado o no

todas las transferencias correspondientes entre partidas todas las modificaciones presupuestarias el presupuesto actualizado no el ejecutado

en cualquier caso estaba clara su intención cuando dijo que el departamento procederá a gastar en este ejercicio como límite este en el que estamos el importe de gasto que tenía asignado en el presupuesto

que presentamos entiende el gobierno en dos mil trece es decir que independientemente de argumentos equivocados independientemente de pretextos y de que no ha pedido

porque va a mantener como criterio lo que tenía en el proyecto de presupuestos que retiró y lo llamativo es que pretende justificarlo diciendo que el gobierno anterior no ejecutó el cien por ciento y entonces yo pregunto si está dispuesta la consejera a cumplir lo que dijo e invertir eso lo ejecutado el año pasado

en este año por su respuesta no va a ser así

porque es imprescindible aumentar nuestro nivel tecnológico y eso no se logra recortando en investigación la competitividad

no con una producción más eficaz además de todo esto hay otro problema importantísimo con estos recortes

en los agentes de la red vasca de ciencia tecnología e innovación

se refería la consejera al presupuesto ejecutado por el gobierno anterior como criterio para este año y yo quiero decirle

y en las convocatorias de dos mil doce que corresponden a ese objetivo gaitek

en su conjunto se concedieron ciento sesenta millónes de euros

cuando el presupuesto de esas convocatorias era

millónes es decir se gastó en conjunto en esas convocatorias

uno coma cuatro millónes más de lo presupuestado

aplicar este año lo ejecutado y gastar no lo que ustedes proponían en el proyecto de presupuestos retirado sino uno coma cuatro millónes de euros más

presupuestado el año pasado están dispuestos mantiene la consejera su palabra no estaría mal nosotros nos conformamos y pedimos hoy en esta proposición

en esta moción que agradezco a eh bildu su apoyo

mantenemos que al menos

se financie lo que había en el presupuesto actualizado si quiere del dos mil doce ni ejecutado

al menos lo que había en el dos mil doce para no disminuir la marcha

año pasado a su disposición también incluimos en la transacción con eh bildu

ayuda a mantener los puestos de trabajo relacionados con esas subvenciones

y en cuanto a la transacción que han firmado el grupo nacionalistas vascos y el grupo populares vascos tengo que decirles que formalmente es una transacción positiva no compromete ese mantenimiento del gasto para este ejercicio y entonces nosotros no podemos admitir esa postura puesto que dice claramente

al mayor nivel posible ese posible deja la puerta abierta

lo que se gastó lo que se invirtió el año pasado no garantiza

en la transacción que hemos acordado eh bildu y socialistas vascos se incorpora

razonable nos parece una buena aportación así que creo que hay elementos suficientes para que otros grupos se sumen aún ahora en la votación a esta transacción

lo contrario de lo que llevan haciendo en el gobierno estos meses

no hacer nada nuevo y anunciar lo que aún no han

pero estamos ya señores pnv a la mitad del ejercicio y si el gobierno no se da prisa no tendrá tiempo siquiera

señores parlamentarios buenos días estamos es cierto en un momento complicado en un momento difícil para las políticas activas de estímulo es cierto para la generación definitiva y uso del conocimiento como estímulo económico

tenemos varias herramientas disponemos los gobiernos disponen de varias herramientas más allá de las subvenciones directas hay instrumentos como por ejemplo la fiscalidad que también

contribuyen a este estímuloy por ejemplo también la compra de tecnología

la compra pública de tecnología innovadora pero viendo las actitudes en las diputaciones

y no vamos a entrar en muchos detalles pero podríamos hablar por ejemplo de gipuzkoa

si ninguna de estas otras herramientas se utiliza si tampoco la herramienta de estímulo directo público el problema y la situación obviamente se agudiza obviamente el problema se hace

directas de carácter público que son objeto de esta proposición no de ley

al grupo parlamentario popular le preocupa profundamente el tijeretazo tan importante que el gobierno vasco ha dado en las políticas de más i como media cabe recordar por no repetirme con la intervención del señor reyes que el gobierno vasco lo que nos planteaba hace muy pocos meses

era aplicar un recorte de un treinta por ciento en términos absolutos en los fondos destinados más i esto supondría como todos ustedes saben perder la oportunidad de generar cerca de doscientos veinte millónes de euros

de euskadi y lo que supondría también dejar de generar como algunos informes y algunos estudios plantean dejar de generar

de alta cualificación y esto solo estos últimos datos que he aportado solo con el tijeretazo aplicado

que viene a ser entorno del treinta y siete por ciento pues bien con esta decisión del gobierno vasco con su apuesta

en detrimento de políticas económicas estratégicas nos alejamos lamentablemente del objetivo de alcanzar el tres por ciento del pib en inversión cierto público privada pero del tres por ciento

más i creemos que con esta actitud del gobierno vasco en caso de consolidarse y de mantenerse

alejaríamos a nuestra comunidad autónoma de la competitividad y de la creación de empleo nos alejaríamos

y nos alejaríamos de la aplicación de resultados por lo tanto con la actitud del gobierno vasco recortando

nos alejaríamos de la suma de capacidades y el propio gobierno perdería liderazgo y perdería confianza entre los inversores privados también es un problema cabe recordar que el plan de competitividad empresarial dos mil diez dos mil trece y el plan de ciencia tecnología e innovación dos mil quince

del pib en dos mil quince en inversión público privada y lo recuerdo porque esa pérdida de confianza de los particulares de los privados de las empresas esa

de semejante manera su aportación desde luego no incentivaría tampoco a las empresas y no supondría un acicate para alcanzar ese tres por ciento por eso decía

al objetivo al cumplimiento de ese objetivo expresado por los documentos por los planes que acabo de enumerar la realidad es que hoy estamos lejos de ese objetivo la realidad es que estamos demasiado lejos pero

a tiempo estamos a tiempo de rectificar y el gobierno vasco está a tiempo de reconducir este

a un acuerdo de transacción con el partido que sustenta al gobierno fundamentándolo en su compromiso de ejecutar las previsiones

dos mil doce e incrementarlas en caso de que fuera posible se menciona en el acuerdo de transacción al que hemos llegado la relajación

esta decisión en una hipotética relajación del déficit público para conseguirlo pero tengo que decirles también que no creemos que sea la única posibilidad se pueden hacer cosas se puede reducir gasto superfluo también para apostar las políticas públicas de

se puede renunciar a lo prescindible se puede renunciar y se debe renunciar y el gobierno vasco debe de hacer también una apuesta decidida por reducir de una manera drástica el gasto público no productivo hay un gasto público productivo

debe de poner el acento en la reducción del gasto público no productivo y reducir las aportaciones

es atacar al gasto público productivo y ahí vamos a estar vigilantes hoy confiamos en su compromiso confiamos en el compromiso expresado por el partido que sustenta al gobierno pero mañana

su incumplimiento si es el caso creo que estamos en un momento en el que tenemos que remar todos a favor en el que tenemos que aportar cada uno desde nuestras posibilidades nuestro conocimiento y nuestra posición política

y para conseguir que euskadi ocupe un lugar protagonista y relevante en el mapa de las comunidades autónomas y en el mapa europeo también de comunidades

que nos avecinamos o que nos encontramos yo creo que no

nos ha hablado de fondos europeos ya mencionaré ese tema más adelante ha hablado que la reducción del presupuesto

sería cierto si lo comparamos con presupuestos sería de un nueve por ciento si lo comparamos con lo ejecutado siendo

el año pasado nos ha hablado del pesi y quiero recordar también que el pesi el plan agenda digital dos mil quince que presentó

ha sido el plan que mayor reducción ha tenido yo creo que en la historia de todos los planes del gobierno vasco y fue aprobado

vuelto a dirimir sobre si un presupuesto actualizado o no

quedaron catorce millónes sin ejecutar para fondos tecnológicos para potenciar nuevas

dentro de la misma viceconsejería y dentro del mismo área nos ha dicho que la

que hemos firmado con el partido popular

pero lo que me llama la atención es que en todo su discurso no ha hecho ni una referencia a las necesidades que tiene el sistema vasco

de actualizarse y de mejorar el partido popular ha hablado de que hay que ir a una reducción del gasto público no productivo yo creo que el compromiso del gobierno vasco

superfluos y tanto también de estructuras pero siempre manteniendo el modelo vasco de bienestar e impulsando aquello que ha hecho que nuestra economía

y dotara a todo el sistema económico vasco de recursos suficientes para poder mantener el modelo vasco de bienestar bildu

por la investigación el desarrollo y la innovación es uno de los pilares que hemos venido llamando modelo vasco de competitividad y una de las características que los distintos gobiernos vascos han venido manteniendo durante los últimos treinta años

una apuesta del partido nacionalista vasco siempre el país vasco ha estado apoyando activamente una estrategia de innovación regional durante los últimos treinta años posiblemente más que ninguna otra región europea

tal como un informe del dos mil once de la ocde decía

el propósito principal de un gobierno de un partido político no puede ser celebrar el pasado y dormirse en éxitos pasados los partidos y gobiernos vascos han de evaluar

la era de la especialización inteligente una época que puede ser menos tolerante con las debilidades del sistema de ciencia y tecnología del país vasco

nuestro sistema tiene debilidades eta hori

ya lo recordó en su día la consejera lo ha vuelto a recordar el señor reyes

es que en este momento los créditos aprobados el último día del dos mil doce son los que están activos

atacar a todo ese presupuesto que parece que no de la misma forma que el

ya se lo he dicho antes se quedó en el ochenta por ciento del presupuesto

la visión y los objetivo que el departamento de desarrollo económico tiene para el área que ahora nos ocupa ya han sido expuestas por la consejera en distintas comparecencias

posteriormente en respuesta en este parlamento habló de la necesidad de

para poder ir a una mayor focalización y eficiencia del sistema

innovación estrategia necesaria para poder seguir acudiendo a esas ayudas europeas o esos fondos europeos que usted decía si no

no podremos acudir a ellas y creo que todos compartimos que tenemos que seguir acudiendo a las mismas

esta misma semana la viceconsejera de universidades e investigación a raíz del informe sobre

de mejorar la eficiencia del sistema son muchos los agentes

de todos los ámbitos que nos indican o han llegado a conclusiones parecidas sobre la necesidad de mejorar el sistema vasco de

y será expuesto en breve en el parlamento por lo que podremos observar las líneas generales y concretas que contiene el mismo

mantener lo que hay redactar los documentos que hay que redactar para mejorar el sistema y apostar por lo que hemos venido haciendo

si la apuesta debe ser por modelos innovadores basados en la ciencia o modelos más basados en la experiencia si podemos o tenemos que apostar por modelos de innovación más

en los que podamos añadir mayor valor añadido a los productos que generamos y generar mayor economía equilibrar el tipo de innovación

será gran parte del éxito del futuro de la economía vasca yo creo que compartimos en gran parte

más i hemos estado hablando de que en este momento parece que hay un parón

el presupuesto para todos estos programas que menciona el señor reyes en su moción

fue menor el presupuesto del dos mil once fue menor que el del dos mil diez y que el dos

eso ha sido así y espero que siga siéndolo pero no solo es una cuestión

de dar los fondos en la medida que los agentes investigadores los necesiten no solo es cantidad sino también es cómo y en qué

para decir que teníamos intención de votar a favor de la moción planteada por el señor reyes compartimos su discurso compartimos su intervención

compartíamos también la enmienda planteada por parte del grupo popular de echo el grupo popular también compartía la moción planteada por el grupo socialista

nosotros pensábamos que efectivamente podría llegarse a un acuerdo entre ambos grupos y nosotros

esa enmienda transaccional finalmente el grupo socialistas vascos y están en su derecho a ello han pactado una transaccional con eh bildu por este motivo nosotros no votaremos a favor de esa enmienda transaccional sino que nos abstendremos y por otro lado y en relación

nos parece creo que como a la mayoría de esta cámara claramente insuficiente y por eso votaremos en contra teniendo además en cuenta

la senda de lo que ha venido haciendo en los últimos años el gobierno de españa en fin no podemos olvidar

absolutamente fundamental para salir de la crisis por estas razones y en conclusión nos abstendremos

a la transaccional firmada entre el grupo popular y el grupo nacionalistas vascos porque pensamos que no aporta nada ni exige nada al gobierno por lo tanto votaremos en contra gracias

gracias señora presidenta bien

el debate se mantenga no solo en el tono sino en la exposición de los grupos dentro de unos límites

un acuerdo de fondo respecto a la necesidad de mantenerla e impulsarla siguiendo con la tradición que tenemos con distintos gobiernos en este país eso está bien el problema es que en el ejercicio en el que estamos y en los que vienen eso

ese es el problema y es lo que estamos hablando y no estamos hablando de programas que se van a presentar de sinergias que hay que buscar como decía la consejera en respuesta a mi interpelación del otro día

no no estamos hablando de eso estamos hablando de que sino mantenemos al menos

del ejercicio pasado va a sufrir el conjunto de la red vasca de ciencia tecnología e innovación

puede haber despidos y sobre todo no vamos a

en un momento de crisis eso es así y es lo que estamos discutiendo yo entiendo señor etxeberria que hay que dar vueltas en fin

porque no hay datos para otra cosa cuando me dice que no se ejecutó yo le he dicho antes y le voy a repetir que

en su conjunto se ejecuto uno coma cuatro millónes de euros más de lo presupuestado más

no le pido siquiera que ejecuten uno coma cuatro millónes más sino lo del dos mil doce

claro pues mire estos programas que le acabo de citar esos programas en la última convocatoria en conjunto mil ochocientos ochenta y cinco solicitudes presentadas

denegadas quinientos cincuenta y nueve es decir no es que las empresas no quieran acudir no es que no se esté ejecutando oiga y si ejecutan porque para cobrar el dinero tienen que acreditar

empleado adecuadamente de acuerdo con las condiciones estipuladas es decir que quinientos cincuenta y nueve no incluyeron unos no serían suficientes y otros no entrarían

en el límite es decir que las empresas sí quieren y necesitan estos programas no solo que políticamente tradicionalmente en euskadi se consideren

ya pues ya me dirá cómo si no recortan gastos de algún sitio si no mejoran el funcionamiento que no han explicado cómo porque en gastos de funcionamiento una disminución una racionalización importantísima en la legislatura

cómo van a cubrir los ochenta y ocho millónes de euros de desfase para este año respecto al año pasado para esa red que no estamos hablando de uno millón de dos de tres estamos hablando de ochenta y ocho millónes de euros

logra mejorando el funcionamiento compensar el déficit

o de gestión al menos porque es imposible y si no yo se lo recordaré a finales de año me comprometo a ello a ver qué me va a decir a ver cómo ha esos ochenta y ocho millónes a ver si ha podido ejecutarlo

que esos ochenta y ocho millónes en fin fíjense hablan de que es una apuesta de este gobierno

yo tengo que decirles que creo que quieran hacerlo pero no priorizan adecuadamente y en política cuando se gobierna

las consecuencias y ustedes han priorizado han decidido recortar

este martes por los ochenta y ocho millónes digo en

se han aprobado los planes estratégicos del gobierno para el período dos mil trece dos mil dieciséis

que está aprobado que está en marcha que tiene un cuadro de mando para todos estos años y resulta que va al año dos mil catorce no el dos mil trece siquiera

dice el gobierno de planificación oiga pero es que está en marcha es que tiene que cumplirlo un problema enorme al que no entran y es que están recortando fondos recortando programas y queriendo modificar no sabemos todavía cómo planes están haciendo eso sin tener

en un sistema se puede quitar una pieza si alguien considera que puede meter otra que ayuda a que el sistema funcione mejor pero quitar piezas y no reponerlas quitarlas antes de esperar a tener las nuevas eso es mal gobierno y para lo que nos ocupa hoy es un perjuicio para

yo solo quiero decir que el grupo socialista pacta

con otros grupos y apoya las iniciativas que provocan soluciones

señor reyes en el fondo ustedes también son responsables de que no haya medios porque son corresponsables también de que no haya presupuestos porque podrían haber aprobado con estos señores los presupuestos y podían haber sacado adelante unas cuentas que

aquí está muy bien que haya que cumplir con no sé qué estadísticas a presentación de proposición no de ley pero tienen que mantener cierta coherencia yo a upyd también al señor maneiro decirle que a veces en la vida señor maneiro hay que mojarse a veces en la vida hay que tomar decisiones

extremo rigor de que no vota porque está bildu pero con mi abstención permito que salga lo que bildu quiere y no voto lo que quiere el partido popular y el partido nacionalista vasco porque no me gusta estoy en territorio de nadie que no es verdad porque con su abstención activa

que la iniciativa de bildu salga adelante con lo cual una cosa es el discurso y una cosa el mensaje y otra cosa es la realidad y

a veces en la vida conviene mojarse nosotros lo

de otros grupos parlamentarios nosotros no vamos a votar la iniciativa del partido socialista acordada y transada con bildu no porque nos parezca que está mal porque probablemente podríamos aprobarla

no creemos que precisamente quienes son firmantes de esa iniciativa ni apuesten por la innovación ni apuesten por el futuro

lamentamos que el partido socialista sí confíe en bildu sí crea en la política económica y de desarrollo económico de euskadi

y en un compromiso expresado por el gobierno porque aquí estaremos para comprobar que se cumple muchas gracias

dicho que nuestra enmienda no aporta ni exige nada al gobierno vasco no estoy de acuerdo yo creo que aporta

la no presentación de ninguna enmienda que ha hecho el señor maneiro o más

entiendo que aporta más de lo que ha hecho usted que no ha presentado ni una enmienda siquiera nosotros por lo menos hemos intentado mejorar y que es que

tenemos claro el compromiso y si hablamos de cifras yo creo que se lo dijo no no creo estoy seguro se lo dijo la consejera

le habló que con los ciento cincuenta millónes del anteproyecto de presupuestos más los

que se pretendía invertir a través del eve en

más una probable relajación del déficit no solo se iba a conseguir ejecutar lo mismo que el año dos mil doce sino que se iba a superar eso es lo que le contestó si no le gusta la respuesta

que el objetivo del gobierno no era ejecutar lo del dos mil doce

esa fue la respuesta que le dio el gobierno y cuando nos pregunta cómo podemos mejorar

los distintos informes que muchos de ellos recibidos en el parlamento o

están claramente identificados y de alguno de ellos ya hemos hablado en este pleno porque la consejera

y evaluación de sistema y si se leen ustedes los

qué es lo que hay que hacer para mejorar nuestro sistema también quiero recordarle que fueron ustedes los que multiplicaron la deuda y los que pudiendo haber presentado un presupuesto para el dos mil trece renunciaron a ello

fotografiado mejor y que pudiendo haber presentado alguna enmienda a los presupuestos o al anteproyecto de presupuestos presentado

no presentaron ninguna enmienda a la parte de gastos donde podríamos ver también quizás

este incremento de presupuestos que ustedes pretenden de dónde lo podríamos sacar yo creo que está bien

nuestra opinión se lo decíamos la legislatura pasada la cuestión no es gobernar mirando por el retrovisor y espero que el partido socialista tampoco haga

porque ya no es la primera iniciativa en este sentido

insistiendo en que se mantengan ciertas cosas de la misma forma como diciendo que esto es el máximo que se ha podido conseguir nosotros creemos que se puede mejorar y esa es nuestra intención

como les decíamos que no gobernaran mirando por el retrovisor les insistimos ahora en que no hagan oposición

que vean cuáles son las necesidades del sistema vasco de ciencia y tecnología

ayuda de todo el mundo a mejorar el sistema que tenemos porque tal y como decía el señor isasi es clave

de nuevo con su permiso desde el escaño para decirle al señor semper

al menos tanto como los demás es upyd y hoy volveremos a hacerlo y nos abstendremos por las explicaciones que he dado nos abstendremos ante una enmienda de transacción firmada entre el grupo socialista eh bildu precisamente porque el grupo socialista ha decidido como en otras ocasiones y está en su derecho de pactar algo con eh bildu en ese caso y como siempre hemos hecho nosotros

mantenemos nuestro criterio y nuestra coherencia no permitimos nada es una abstención abstención no es el apoyo de nada por lo tanto no permitimos nada y si falta algún parlamentario en esta cámara en la votación de hoy en todo caso sería responsabilidad

de este parlamentario no de un servidor nosotros nos abstenemos

compartíamos la moción planteada por el grupo socialista del mismo modo que usted señor semper compartía la moción planteada por el grupo socialista

no planteamos enmienda porque compartíamos la moción planteado por el grupo socialista ustedes representantes del grupo nacionalista vasco

sino para tratar de perjudicarla para tratar de reducirla para tratar de que sea menos exigente y por lo tanto como ustedes han firmado esa enmienda con el grupo popular que no dice básicamente nada y que es claramente insuficiente nosotros votaríamos en contra hombre más extraño es la posición del grupo popular que efectivamente esta de acuerdo con la moción planteada del grupo socialista está recogida su enmienda de adición y sin embargo vota en contra y no solo eso

sino que además firma una enmienda de transacción con el grupo nacionalistas vascos en la que no cree

en conclusión en coherencia a nosotros no nos gana absolutamente nadie y no trate usted de sacar cabeza en este asunto coherencia
absoluta mantenemos el mismo criterio que siempre gracias eskerrik asko maneiro jauna amaitu da eztabaida eta bototara

txanda barrio jauna zurea da ekimena aurkeztu eta aldezteko buenos días gracias señora presidenta señoras y señores parlamentarios

en la interpelación realizada a la señora consejera de educación y cultura queríamos dar a esta iniciativa un enfoque constructivo y de aportación al esfuerzo que el gobierno vasco y la diputación
foral de bizkaia van a tener que realizar mesedez isiltasuna

van a tener que realizar en la renegociación en el acuerdo de mil novecientos noventa y uno con la fundación solomon guggenheim de nueva york en relación al museo guggenheim bilbao y que

a finales de dos mil catorce recordábamos el pasado viernes veinticuatro que el dieciocho de junio de dos mil doce es decir hace un año exactamente

una resolución en relación con el informe de la ponencia de análisis y evaluación de la trayectoria del museo de bilbao por esa ponencia parlamentaria

la cultura la política la universidad la crítica la dirección de museos pasaron galeristas evaluadores de políticas públicas comisarios

y ese testimonio sirvió de base para la redacción y aprobación de un dictamen claro completo sobre fundamentalmente las posibilidades

y la parte americana tienen que negociar para finales de dos mil catorce como recordábamos también la comisión realizó en su informe una serie de consideraciones aprobó diecinueve recomendaciones que persiguen que la

la parte vasca vea reforzada su posición con el fin de superar algunos déficits detectados normales en la vida inicial de esta

algunos déficits detectados en su posición estratégica en el conglomerado guggenheim en su gestión

etcétera la consejera ya anunció que en la respuesta a la interpelación que hasta ahora las instituciones que forman la parte vasca el gobierno vasco y la diputación foral de bizkaia han trabajado por separado y que ahora en junio ambas instituciones elaborarán una reflexión común establecerán una estrategia común mediante reuniones que comenzarán

nos informó la señora consejera está claro que el dictamen

debe de jugar un papel tanto en la consideración inicial y puesta en común de la parte vasca como en las propuestas de los acuerdos para la negociación

determinadas cuestiones esenciales que la parte vasca debe abordar de forma ineludible el dictamen y la posición indicada por la consejera comparten un objetivo común desde nuestro punto de vista

como indicó la señora consejera reforzar el guggenheim vasco y propiciar un futuro de mayor dinamismo y de mayor impacto cultural social y económico bueno pues las dos estrategias la que debe llevar la parte vasca y la que

tienen que reforzar desde luego esa situación y esa posición de ese mayor

más profundas en lo que es la realidad guggenheim es decir nuevas bases y trabajo sobre una mejor posición del museo guggenheim bilbao en la siguiente andadura de la pinacoteca bien es preciso hacer un repaso a lo que fue un clarificador informe de ponencia

y sobre todo las recomendaciones buscan dar potencia a la parte vasca en la futura negociación con los americanos y se realizaron consideraciones de muchos tipos es decir sobre el éxito económico que hay que reconocer el éxito del museo guggenheim el éxito económico urbanístico turístico del museo guggenheim bilbao y

evaluación de su impacto a otros sectores sobre el contexto es decir y la naturaleza del acuerdo firmado en mil novecientos noventa y uno los tiempos han cambiado y han cambiado mucho ese acuerdo firmado entre el gobierno vasco diputación foral de bizkaia y solomon r guggenheim

la parte vasca se ha fortalecido el guggenheim bilbao hoy no necesita tutelas hoy lo que necesita es moverse en la colaboración con

bien también se consideraba sobre la necesidad de adecuar el acuerdo

y de conseguir una cosa importante de la que todo el mundo habla que es que el museo guggenheim bilbao sea núcleo estratégico

no es baladí y no es ambiciosa es real es realista en relación con la potencialidad con la fortaleza

artística guggenheim también hablábamos también hablaban las consideraciones de la ponencia sobre el avance de los criterios de mejora perfeccionamiento

puntuales perceptibles en relación con lo que ha sido la andadura hasta ahora también sobre la necesidad de profundizar en la relación del museo guggenheim bilbao con el arte vasco

con la creación artística y cultural propia eso todavía es una asignatura pendiente y ahí hay mucho terreno de juego y es el elemento fundamental de lo que tiene que ser también

la ponencia se hablará se negociará pero hay que tenerlo desde luego en cuenta como un elemento fundamental que muchas

que comparecieron en la comisión lo pusieron de manifiesto también en relación con cuestiones importantes que tienen que ver con cómo es cómo se conforma cómo se define el patronato del propio

se hicieron reflexiones interesantes que yo creo que también es bueno que se tengan en cuenta en el proceso de elaboración de los postulados de la parte vasca también sobre la dimensión didáctica sobre la formación de los recursos humanos en relación del museo sobre la necesidad de enmarcar el museo guggenheim bilbao en el contexto de políticas culturales de la administración vasca siendo un museo privado sostenido con dinero público en relación con ese tema yo creo que tiene que

en ese contesto de políticas culturales de la administración vasca de una manera más decidida

pero se da una orientación que yo creo que es clave a la hora de mantener la posición y también se hablaba en las consideraciones y recomendaciones sobre una posición fuerte y decidida en la nueva

la parte vasca tiene que demostrar fortaleza en esta negociación también se hacía referencia en esa ponencia en ese dictamen de la ponencia

por parte de la parte americana de algún punto del acuerdo de mil novecientos noventa y uno sobre todo en relación con la rotación de fondos de guggenheim y el reforzamiento de la colección

en determinados incumplimientos o debilidades o rebajas de las expectativas que se planteaban en mil novecientos noventa y uno y ahora desde luego eso hay que abordarlo desde otro punto de vista y además de estas consideraciones pues una serie de recomendaciones hasta diecinueve en coherencia con esas consideraciones están a disposición de todos ustedes todos las conocen dan fortaleza al perfil vasco del museo en su nueva andadura tienen que dar fortaleza a ese perfil vasco a parte del internacional por supuesto del que siempre ha jugado pero

estamos en un momento crucial en la negociación la parte vasca tiene que hacer su reflexión tiene que hacer sus planteamientos y el dictamen de la ponencia

pautas de actuación y ahí está y tiene que ser reconocido por ello nosotros agradecemos a la consejera su consideración con el trabajo de la ponencia y entendemos que

se debía dar desde el parlamento vasco que es lo que estamos haciendo ahora un impulso al dictamen para que formara parte del proceso negociador

que debe emprenderse inmediatamente es decir esta iniciativa se hace con un espíritu constructivo y de ayuda de ayuda del parlamento vasco a la parte vasca sobre la base

y porque este éxito éxito guggenheim se refuerce se consolide vaya a más es decir es que se puede y se debe ir a más se puede mejorar

mejor para todos para el arte para la cultura para la sociedad vasca para nuestra internalización cultural es decir está bien claro que ahí hemos visto elementos de mejora de un éxito que todos vamos a reconocer también en esta iniciativa es el momento ideal para la aprobación de este texto de esta iniciativa y por ello la idoneidad del trabajo realizado por la ponencia se ha anunciado que comienza el trabajo de las instituciones que conforman la parte vasca para fijar una posición común y en ese sentido esto tiene que ayudar guggenheim bilbao

el planteamiento que tenemos que hacer sobre él y desde luego nuestros compromisos presupuestarios hacen que forme parte de nuestra responsabilidad pública de nuestra responsabilidad política

nos queremos preocupar por ello y lo hacemos de esta manera es decir esta aportación se debe de sumar a los informes que

la otra parte la diputación foral de bizkaia aporte al proceso y al corpus unitario que conforme la parte vasca en la negociación con los americanos por ello nosotros hemos planteado esta moción nosotros décimos en la moción que el parlamento vasco asume las consideraciones y recomendaciones del dictamen de la ponencia para el análisis

e insta al gobierno vasco a que las incluya en el proceso negociador

de gestión que deberá firmar en diciembre del dos mil catorce es una postura clara yo creo que va en consonancia

debatido el otro día en la interpelación realizada a la consejera de educación política lingüística y cultura en ese sentido yo creo que es innegable que lo que quiere esto es aportar

no ver otra cosa que elementos de ayuda y de consideración de temas de cuestiones los planteados en la ponencia que van a ser ineludibles que son esenciales que se van a tratar sí o sí o sea en ese sentido yo creo que lo que hacemos aprobando

esta moción es desde luego dar un paso adelante para finalizar por ser un poco ilustrativo

dictamen el informe de la ponencia qué decía la prensa en el momento yo creo que es algo de referencia que todo el mundo interpretó

que era positivo que iba a ayudar pues yo voy a decir lo que decían tres medios de comunicaciones distintos y decían bilbao deberá renegociar

según el parlamento vasco eso es lo que queremos negociar de tú a tú con nueva york el próximo convenio

de comunicación decía el parlamento vasco pide más peso de la parte vasca en el acuerdo guggenheim

eso pedimos más peso en el nuevo contexto después de veinticinco años otro medio de comunicación decía que el parlamento vasco cierra el dictamen que pide un guggenheim

bueno es otra forma de ver las cuestiones pero lo que queremos es eso que la parte vasca

dar elementos de ayuda y de apoyo y que desde luego entender que el contexto

muchas cosas que decir en ese futuro acuerdo con los americanos muchas gracias eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz